artículo diez adopción de acuerdos con carácter general los acuerdos de la mesa se adoptarán por unanimidad de las partes que la integran

de al menos una de las organizaciones pertenecientes al grupo sindical sindikatu batzuek esan zuten zer zen hori excepcionalmente salbuespen moduan eta horrek sortzen zuela

arratsalde on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea el diálogo social según la organización internacional del trabajo es uno de los diez indicadores

debieran participar activamente en la toma de decisiones respecto a las condiciones de trabajo y en la definición de las políticas públicas y ello porque se considera que la libertad de organizarse

constituye un ingrediente esencial para garantizar la dignidad de las trabajadoras para elkarrekin podemos el diálogo social

donde potenciar la democracia social y económica lo que implica que solamente con el respeto en los procesos y contenidos por parte de los gobiernos es posible fortalecer un desarrollo sostenible para nuestro grupo parlamentario es fundamental que con el ámbito de las relaciones laborales se establezca un debate y a ser posible una toma de decisiones compartidas de las políticas públicas con agentes sociales siempre que estas decisiones

la calidad de vida de las trabajadoras y de la ciudadanía en general sin embargo después de que el gobierno vasco y confebask suscribieran el pasado dieciséis de abril el acuerdo marco de colaboración por el empleo

como ya denunciaba mi compañero jon hernández en esta cámara

el único diálogo que funciona es el bilateral entre gobierno y patronal un modus operandi claramente autoritario

de entender el diálogo social el gobierno vasco no puede diseñar políticas industriales laborales y sociales sin contar con las centrales sindicales mientras por otro lado le responsabiliza de la falta de acuerdos

que ese acuerdo dejaba en manos de la patronal acciones en áreas como la intermediación laboral la formación para el empleo o la orientación laboral que deberían llevarse a cabo por los servicios públicos de empleo es decir por lanbide y lo hacía creando un marco que permite la financiación a la patronal para el desarrollo de esas acciones

claramente clientelista y hablo en pasado la moción presenta por nuestro grupo este acuerdo se paró y no fue

y echara marcha atrás sino porque tanto la presión sindical como la política le han obligado a parar lo que era a todas luces un atropello en este contexto el pasado veintitrés de julio el gobierno envió por correo el proyecto de decreto para la institucionalización del diálogo social en la comunidad autónoma de euskadi dando hasta el siete de septiembre como fecha tope para que la organizaciones sindicales y empresariales

facilitando la participación al mandar el proyecto de decreto en pleno verano y con unos plazos muy escasos para que pueda ser valorado y analizado y además para que existan aportaciones sustanciales por parte de las diferentes centrales sindicales y si bien el dialogo social debe ser inclusivo y fomentar la participación entre el gobierno la patronal

diferentes sindicatos de euskadi no es este el caso este gobierno vasco no está explorando la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas

no atiende a las legítimas reivindicaciones de las trabajadoras este proyecto de decreto plantea un modelo continuista y obvia cuestiones clave

hasta el momento desarrollado el resultado es una propuesta de decreto que no respeta la representatividad de los agentes sociales además de incluir

es democrática y que está fundamentada en tres cuestiones la primera la falta de participación de la representación obtenida por la comunidad sindical vasca sin respetar los resultados de las elecciones sindicales la segunda la dudosa fórmula de promocionar

que son obviamente inútiles y en consecuencia llevan a la inexistencia de resultados de esta forma de entender el diálogo social y la tercera la evidencia de un gobierno condescendiente con una patronal con la que firma acuerdos a espaldas de los sindicatos de esta manera el contenido del proyecto del decreto evidencia una falta de voluntad política para el desarrollo de un dialogo social real y una visión formalista

del mismo con el objetivo principal de acompañar y legitimar las políticas públicas de este gobierno neoliberal para empezar

deja mucho que desear adolece de una participación real de todos los agentes sindicales de nuestra comunidad así como de un debate previo tan necesario para la creación de un marco estable y democrático para el diálogo social y nos preocupa la concepción

en torno al diálogo social totalmente devaluada

con las centrales sindicales reduciendo los espacios de actuación que legítimamente les corresponden y dando la espalda a aquellas reivindicaciones que no son de su agrado supone un paso adelante más del gobierno para tratar de restar efecto a los resultados democráticos de las elecciones sindicales y un paso atrás más para la normalización de sus relaciones con los diferentes sindicatos

de decisiones en materia de trabajo y empleo de manera bilateral con la patronal para elkarrekin podemos el modelo de relaciones laborales actual resultante de las sucesivas reformas laborales tanto del pp como del psoe que han venido a reforzar

empresarial atacan debilitan y devalúan la negociación colectiva

un instrumento para delimitar el poder empresarial y hacer que la economía esté sujeta al control democrático a favor de una mayoría social y cuyo objetivo sea velar por resolver los principales problemas que sufre la clase trabajadora en euskadi sin embargo en el proyecto

que el gobierno ha propuesto al regular su composición y toma de decisiones realiza una huida hacia adelante lejos de abordar los problemas señalados institucionaliza un diálogo social neoliberal a la medida de las necesidades de quien lo propone en detrimento de la representación obtenida

que otorgan la representatividad democrática a las centrales sindicales por todo lo expuesto anteriormente diversos sindicatos de nuestra comunidad autónoma

su rechazo ante un proyecto que da la espalda claramente a los sindicatos y que desarrolla un funcionamiento de la mesa de negociación antidemocrático y desproporcionado con la realidad sindical en euskadi desde elkarrekin podemos presentamos una enmienda a la propuesta que hoy nos ha traído el señor casanova y que responde a la necesidad de un nuevo proceso de elaboración

para la institucionalización del diálogo social con la participación de las centrales sindicales y el debate político previo a través de la negociación con los agentes sociales

y cuyo objetivo sea la creación de un marco estable y democrático para el diálogo social y proponemos trabajar en torno a una proposición de ley de participación institucional previamente acordada con los agentes sociales más representativos como fórmula para evitar las arbitrariedades del gobierno a la hora de elegir

emanada de las elecciones sindicales no podemos saltarnos la representatividad debemos respetar el resultado de las elecciones sindicales

las trabajadoras en euskadi este gobierno no puede seguir despreciando la realidad sindical en euskadi mientras desarrolla políticas neoliberales

sean puestos al servicio de los intereses empresariales y no de la resolución de los problemas de las trabajadoras porque de eso estamos hablando

de luchar contra la precariedad de mejorar las condiciones laborales y de garantizar el derecho de cualquier trabajadora en euskadi a defender su dignidad laboral

la última vez que debatimos en este parlamento sobre la mesa de diálogo social nos quedó muy clara la postura de eh bildu con respeto a la misma

por tanto a mí y a nuestro grupo no nos ha sorprendido la presentación de esta iniciativa en la que insta la retirada del proyecto de decreto para la institucionalización del diálogo social en nuestra comunidad autónoma

la intervención que han tenido desde elkarrekin podemos para ello el grupo proponente utiliza los argumentos que se han dictado desde esa atalaya que le condiciona y que les controla y que hasta incluso les desautoriza y critica cuando llegan a acuerdos por ejemplo para instar una subida generalizada de salarios le recordaré nuevamente hoy

las políticas públicas de empleo y de reactivación económica deben ser acompañadas e impulsadas mediante el diálogo social siendo necesario para el impulso de este diálogo social

y reforzar el sistema vasco de relaciones laborales por tanto y a pesar de las dificultades y obstáculos con los que nos hemos ido encontrando por el camino

la vía de la concertación y del diálogo social porque consideramos que este es el mejor instrumento para la concertación de las políticas públicas en materia socio laboral entre el gobierno y los agentes sociales tal es así se lo dije en mayo se lo repito hoy

del gobierno el impulso de este diálogo social para cumplir con ese fin que acordamos

tripartito no sé si ustedes entienden lo que es el carácter tripartito

para la participación de los agentes sociales que estará integrado por los representantes del gobierno vasco por las organizaciones sindicales y por las

su voluntad de participar institucionalmente en el mismo el diálogo social todo tipo de negociación consulta o intercambio de información entre las personas representantes de los gobiernos de las empleadoras y de los empleadores y de las trabajadoras y trabajadores

la propia organización internacional del trabajo considera el diálogo social como el mejor mecanismo para promover unas mejores condiciones de vida y trabajo y parece que eso lo compartimos ya después vienen las diferencias y los matices porque sabemos que así se puede promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y conseguir un trabajo de mayor calidad y revertir la precariedad

de impulso del diálogo social y de concertación de la política pública a lo que responde

es objeto de debate en este pleno porque su objetivo no es otro que consolidar la concertación social mediante la institucionalización del diálogo social permanente

que lo que va a dar es otorgar garantías jurídicas al diálogo social y con la que se busca blindar dicha mesa

lo que pretende el decreto es instaurar definitivamente una fórmula de concertación social

que será tripartito y por tanto las materias concernidas tienen que debatirse y aprobarse por consenso entre las tres partes no existiría la bilateralidad

por el que apuestan algunas organizaciones sindicales pero que también es un camino que sigue la patronal y que deberán actuar todos ellos como agentes sociales

que aunque no obliga a los agentes sociales a participar sí tiene vocación de que estén todos tal es así que el propio decreto dice que quien no se incorpore ahora lo podrá hacer

podrá entrar durante el ejercicio en curso se abre la puerta tienen que querer cruzarla se pretende canalizar la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales en los procesos de diseño y en su caso

o que afecten a las relaciones laborales y a la negociación colectiva como así de aquellas otras cuestiones que en el plan de trabajo las partes identifiquen en el plan anual de este modo entre sus funciones

pronunciarse sobre planes estratégicos y planes departamentales del gobierno vasco así como sobre los proyectos de ley y normas de carácter reglamentario que determinen en el plan

y fijar criterios con la finalidad de que sean tenidos en cuenta

afectadas decisiones que serán vinculantes para el ejecutivo vasco

de las partes nadie debería de olvidar que el principal objetivo del diálogo social no es otro que promover el logro de un consenso de un acuerdo y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo para lograr concertar soluciones a cuestiones importantes

a toda la ciudadanía por todo esto los socialista vamos a seguir asumiendo con absoluta lealtad y convencimiento los acuerdos que se alcancen en esta mesa de diálogo social por mucho que

y otros crean que no da frutos como hemos venido haciendo con los acuerdos que se adoptaron en el dos mil dieciséis y en el dos mil diecisiete por cierto

que no ha habido participación y que se ha presentado con un plazo tan corto

los socialistas nos vamos a seguir esforzando para sumar para buscar acuerdos y nos vamos a mantener firmes en la defensa de esta concertación como método de trabajo y lo vamos hacer aprovechado todas las herramientas que actualmente

y lo queremos hacer y se lo repito de la mano de todos los agentes sociales queremos seguir contando con todos sin excepción a pesar de que los clásicos ausentes menosprecian de forma continua el acuerdo y la concertación como método de trabajo que menosprecien

aunque hasta ahora no todas las centrales sindicales hayan mostrado la misma voluntad nunca es tarde se lo dije en mayo se lo repetiré ahora y cada vez que ustedes traigan este asunto

la capacidad de diálogo por todo ello hoy el grupo socialista junto con el nacionalista lo que le va a pedir al departamento de trabajo es que culmine

que es un gran paso contar con este decreto porque sin esta participación y sin la concertación

e igualitario y es verdad que queremos las cosas por consenso y que la forma de funcionamiento de la

es por unanimidad pero también es cierto que no aceptamos vetos y de otra manera lo que se pide es que como mínimo haya acuerdo en las tres partes seguramente esto sea lo que ustedes no consideran democrático

no se puede pretender vetar donde no se está y si se quiere aportar se tiene que participar yo cuando me dicen que no hay una invitación a participar les digo que siempre la ha habido pero sí es cierto que confió y creo en lo que han dicho algunos portavoces de forma previa y ya repitieron en mayo no quieren hacer nada y estoy convencida hay algunas centrales sindicales que no quieren hacer nada y dicen el reloj a cero

otras versiones por tanto el objetivo en este momento está en entrar en aquellos cauces de negociación tripartita de concertación tripartita nos quejamos de la bilateralidad pero cuando instauramos un modelo tripartito tampoco es suficiente

si nos ponemos a mirar el informe del consejo vasco de relaciones laborales

y siete de cada diez convenios colectivos firmados este último año en el país vasco lo fueron por centrales sindicales que sí pertenecen o sí participan

también tendríamos que ver si la incapacidad de diálogo en esta mesa no tiene que ver también con un posicionamiento concreto que las centrales sindicales en este momento están haciendo para su propia opción política

egin ziola jaurlaritzari cuarta vez que debatimos señor casanova sobre este asunto en lo que llevamos de legislatura vamos a capítulo por periodo de sesiones y estando a mitad del mandato

nos quedan otros cuatro no nos incomoda como ha comentado alguna vez muy al contrario

me apasiona somos un partido firme defensor del acuerdo del diálogo y de la palabra principios y valores que aplicamos en todos los ámbitos de trabajo y participación

para nosotros el encuentro el acuerdo y la participación no son palabras vacías como decía en euskera creemos en el diálogo social en la importancia que tiene

laborales y por eso nuestro compromiso plasmado en el acuerdo de gobierno

apoyando un decreto plenamente democrático que pretende institucionalizar el diálogo social por cierto uno de los mandatos que este parlamento aprobó en su sesión de diez de mayo he mencionado la palabra democrático y es ahí donde quiero situar el debate y me gustaría utilizar

únicamente a la defensa de su constitución el fuero de bizkaia pues bien yo

única cuestión en esta primera intervención y por ello elevo respetuosamente a vuestra augusta consideración la de esta cámara mis ardientes votos dirigidos únicamente a la constatación del carácter esencialmente democrático de la posición que hoy defiendo

el partido nacionalista vasco se presentó a las elecciones del veinticinco de septiembre del dos mil dieciséis

etcétera hablábamos de principios inspiradores y su materialización en compromisos iniciativas y actuaciones uno de esos principios inspiradores habla de la política de empleo y de cómo esa política debe tender a propiciar la consecución de un marco

y las empresas consolidando un marco permanente de diálogo y negociación entre los agentes sociales y reforzando el sistema vasco de relaciones laborales

para ello apostábamos por desarrollar instrumentos y espacios de colaboración permanente

entre el gobierno y los agentes sociales en un intento de conseguir su máxima participación y colaboración en la definición y seguimiento de las políticas económicas y de empleo

y ese compromiso constituye también el contrato entre las personas que confiaron en nosotras y nosotros esas personas exigen también

ese es nuestro mandato democrático y también nuestro aval democrático el veintiuno de noviembre del dieciséis firmamos con el partido socialista de euskadi el acuerdo programático

más convivencia y más y mejor autogobierno el diálogo social no se disuelve en ese acuerdo se refuerza así se recoge

en materia socio laboral entre el gobierno y los agentes sociales a tal fin se creará se dice un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional

que como ha dicho la señora castelo manifiesten evidentemente su voluntad de participar institucionalmente en el mismo ese órgano es la mesa por el diálogo social una mesa que tiene tres actores todos son importantes

defendemos su permanencia porque para nosotros ese foro es un elemento participativo y democrático que posibilita el acuerdo hemos estado siempre en él y seguiremos estando

banatzen gaituena baino gehiago da eta ese es nuestro compromiso nuestro mandato y nuestro aval democrático

cuyos planteamientos respetamos y valoramos y esta cámara ejerce ejerce a mi juicio

de impulso al gobierno en el ejercicio de esa función hemos tratado en esta legislatura tres proposiciones no de ley sobre esta cuestión la primera

bildu debatida el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete que terminó aprobando un texto suscrito por el partido socialista

solemos recordar a menudo el segundo y el tercer punto del acuerdo la necesidad de acometer en el marco de la negociación colectiva una subida de salarios y el acuerdo de estructura de enero de

pero del que no podemos olvidar el punto primero que nos hablaba de un modelo de relaciones laborales que garantice el equilibrio entre los agentes sociales

una segunda proposición no de ley a iniciativa de euskal herria bildu debatida el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete ya se ha hecho referencia a ella nosotros no presentamos enmienda entendimos que esa iniciativa era una distorsión de un buen acuerdo vigente y una devaluación

reivindicábamos el texto del amplio acuerdo del veinticinco de mayo el señor casanova no obtuvo el respaldo democrático de este parlamento para su nueva propuesta una tercera proposición no de ley a iniciativa de elkarrekin podemos debatida el diez de mayo del dos mil dieciocho

no consiguió ningún apoyo más allá de los propios a su iniciativa la enmienda del señor casanova tampoco consiguió ningún apoyo

y el partido nacionalista vasco que sí fue aprobada en su apartado segundo insta al departamento de trabajo y justicia a consensuar y aprobar la normativa que regule las funciones los contenidos y la metodología de trabajo de la mesa de diálogo social así de claro mayo del dos mil diecisiete diciembre del dos mil diecisiete mayo del dos mil dieciocho

no les parece que esto es un impulso esencialmente democrático a modo de conclusión nítidos compromisos asumidos en programas electorales

materialización en concretas iniciativas en un programa de gobierno aval e impulso derivados de reiterados acuerdos parlamentarios

dice el señor casanova dice usted señor casanova en la justificación de la iniciativa de hoy que hoy debatimos y le voy a citar

el gobierno este gobierno debe actuar en favor de la mayoría y no a favor de una élite económica señor casanova

yo puedo constatar que este gobierno actúa en favor de la mayoría y con respaldo y además con respaldo democrático de la mayoría

constatado el carácter esencialmente democrático de la posición que hoy defiendo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

señor casanova desde el grupo popular vamos a votar en contra de la proposición no de ley que nos ha propuesto hoy sobre la retirada del proyecto decreto de institucionalización de la mesa de diálogo social

no compartimos ninguno de los extremos que usted recoge en su propuesta

estoy seguro porque mire analizando

una clara situación de recuperación económica creo que es término que pone exactamente en la justificación de su pnl y en la tribuna ha dicho que estamos saliendo de la crisis

eso es absolutamente mentira eso podría ser hace unos meses hoy no

la desaceleración después veremos qué es lo que viene y con los tintes de quienes dirigen nuestra política macroeconómica pues el abismo seguramente

también lo comparte conmigo estoy seguro luego la primera de las premisas ya es falsa la segunda viendo los discursos de esta mañana sobre la legitimación de quienes usted representa en su proposición porque aquí ha hablado mucho de sindicatos pero en la justificación de su propuesta habla de ela y lab que son los representantes del sindicalismo vasco yo me pregunto

de los trabajadores obviamente los trabajadores por supuesto los trabajadores por cuenta ajena del total de los trabajadores por cuenta ajena que tenemos en euskadi

qué porcentaje de trabajadores por cuenta ajena vascos acuden a las elecciones sindicales menos de la mitad usted y yo lo sabemos cuarenta y pocos por ciento más o menos según las últimas estadísticas de las últimas elecciones sindicales que hubo ustedes esta mañana votaban con el partido nacionalista vasco diciendo que cuando menos del cincuenta por ciento de la mitad de los electores acuden a las urnas ya es representación y lo que se llega a esas urnas no es legítimo

no tiene por qué tener ningún tipo de legitimidad ni jurídica ni democrática por lo tanto los sindicalistas vascos a los que usted

carecen de un porcentaje superior al que esta mañana debatían ustedes que tuviera legitimidad o no legitimidad

está defendiendo los intereses de alguien que no tiene legitimidad democrática ojo según su propio criterio de argumento que yo desde luego no comparto porque yo entiendo que el voto es libre

y nos gusta que cada uno cuando tenga la oportunidad de votar y sea llamado a las urnas

a las urnas vaya y vote si quiere y si no quiere que no vaya y que no vote y que cuando va y vota vote libremente eso es lo que nosotros defendemos no que defienden ustedes por lo tanto insisto debiera usted retirarla

sino simplemente porque sus argumentos de esta tarde se contradicen por completo con los que su portavoz ha defendido

carecerían de toda legitimidad yo

en la representación de algunos de los trabajadores de euskadi

famoso marco de relaciones laborales vasco por qué vasco y no vitoriano por qué vasco y no de jundiz

resulta que los resultados de las elecciones sindicales son diametralmente diferentes en función del sector económico al que nos podamos estar refiriendo

donde se ejerza ese derecho al voto y en función del sector de que esos representantes trabajen a gran empresa o una pequeña empresa

no lo comparto y usted tampoco porque cuando son los del otro lado de la mesa de diálogo social es decir los representantes de las empresas

de esos sindicatos vascos es criticar su legitimidad porque dicen que no representan a la totalidad que territorialmente no representan al empresariado vasco

la posición que esos representantes de los empresarios vascos tienen en esas mesas por lo tanto por favor utilice los mismos argumentos para mirarse al ombligo

porque creo que eso sí es parte del juego democrático

la posición de esos dos sindicatos pero lo que no me gusta es lo que hacen

de sus condiciones laborales de la lucha contra la precariedad de la lucha contra la brecha salarial de sus condiciones laborales más concretas de miles de derechos que los trabajadores

y de otros países tienen y que no están suficientemente desarrollados pero no lo hacen porque se dedican a hacer política se dedican a jugar con otro tipo de cuestiones y eso las relaciones cuando se tienen que sentar a una mesa una mesa en la que por cierto este asunto se debatió que es la de consejo de relaciones laborales

y ahí está la postura de los empresarios que dicen que a pies juntillas

lógico la de dos sindicatos que dicen que están literalmente de acuerdo con el contenido del decreto a los que ustedes no consideran y que ningunean en su discurso y la de otro sindicato que dice que él ya ha presentado sus alegaciones y que no se le han escuchado hay otro más mayoritario tal vez

igual ese es precisamente el problema por el que el diálogo social no funciona pero me estoy centrando mucho con usted y me queda elkarrekin podemos señora garcía usted

una proposición de ley no me fastidie por dios no le dé ideas al señor lehendakari

una justificación un reconocimiento de legalidad

y presenta esos mismos textos bajo la forma de proposición de ley de los grupos si usted ya le dice y pretende que le apoyemos todos a que presente proposiciones de ley lo primero que te va a hacer la señora presidenta es convocar a la

básico del derecho parlamentario yo no puedo tampoco apoyar la postura ni la enmienda que han mantenido los dos

el mayor empresario vasco entendiendo como empresario como responsable de la mayor empresa vasca no de pib pero sí desde luego de números de trabajadores es el señor urkullu el gobierno vasco es el mayor empleador

de euskadi sus relaciones no personales evidentemente sus relaciones con los representantes de los trabajadores son nefastas luego yo no puedo mantener en ningún momento un acuerdo que diga que estamos de acuerdo en qué bien lo está haciendo el gobierno con las relaciones pues no no lo siento

en el ámbito de la mesa de negociación de la función pública

pero es que si me voy al otro lado de la economía y miro la empresa privada pues me encuentro que el paro juvenil se dispara la brecha salarial

los salarios medios bajan no solamente bajan es que nos están situando bastante por debajo que otras comunidades que antes mirábamos por encima del hombro

en esas mesas de diálogo social también el gobierno y por lo tanto vamos a votar que no también a la enmienda a la totalidad que han presentado los dos grupos que
soportan al gobierno muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

evidentemente la representatividad sindical no se mide de forma perfecta porque hay gente que está excluida de la posibilidad de votar en las elecciones sindicales pero se acerca bastante a una

otras instancias presentes en este diálogo social como son las patronales ni siquiera tienen que acceder a ese filtro y realmente pues el como

bien guardado en este país que nadie conoce pero también traeremos una propuesta ya la tenemos registrada al respecto para que se mida de forma objetiva

hombre a la señora castelo tendría que decirle que cuando nosotros pedimos que en una moción anterior en una propuesta anterior

y sí sé lo que es tripartito entre tres partes no hace falta que me

ni que hable de otras atalayas que supuestamente nos vigilan y controlan yo creo que debería de medir un poco sus palabras en algunos temas porque realmente

la décima parte o la centésima parte de autonomía que la que tiene eh bildu para fijar sus posiciones y en este tema en concreto están ustedes por debajo primero de confebask

fíjese hasta qué punto que a sus socios de gobierno se les olvida hasta invitarles a la firma de los acuerdos de empleo se les olvidan las cosas que no les importan los sindicatos

perfecta autonomía en este tema y todos los demás y no creo que usted pueda decir lo mismo

que ponga en valor mis existencia en estas cuestiones porque no son cuestiones menoras

porque estamos hablando de empleo estamos hablando de precariedad estamos hablando de brecha salarial estamos hablando de accidentes laborales y por tanto no solo

tengo que reconocerles a ustedes que a veces es que nos obligan a entrar en este tema nos obligan cuando hicieron el acuerdo

o nos obligan cuando hacen un acuerdo sobre diálogo tripartito que comparte yo creo el adjetivo

no estamos en contra del diálogo social ni tampoco del diálogo social tripartito estamos en contra del modelo de institucionalización que ustedes han planteado y yo en la parte del programa que ha leído porque entero igual lo leí en su momento pero no me lo tengo memorizado pero en esa parte usted nos ha leído no hace ninguna mención a que esa institucionalización de diálogo social pase

y dar a una minoría la posibilidad de aprobar acuerdos en nombre de alguien para cuya representatividad no tiene ningún título ni ningún derecho

en su programa el señor lehendakari en los discursos de política general

con los sindicatos que no creen en el marco vasco de relaciones laborales que son los únicos con los que actualmente tienen interlocución después de haber dinamizado los puentes con los demás porque yo me

todos los sindicatos tiene perfecta legitimidad y defiendo la legitimidad de todos y es más

que han aceptado participar en este modelo de diálogo social lo hacen desde su autonomía respeto esa autonomía y doy por supuesto que lo hacen de buena fe creyendo que así defienden los intereses de los trabajadores yo eso no lo voy a poner en duda pero entienda que hay una representación y que cada uno tiene el peso que tiene y yo le vuelvo a decir

por lo menos teórica por el marco vasco de relaciones laborales se entiende que ustedes tengan que dar pie a este modelo de diálogo social por qué y esa es la última parte de la intervención sí quería referirme que antes

pues entre otras cosas para que ustedes desde madrid el partido popular que representa lo que representa aquí en este país también en legitimidad pero en franca minoría no nos puede imponer una reforma

de la que usted mismo se quejaba no sé si con mucha coherencia pero que se queje de la precariedad de la bajada de los salarios después de que su partido haya impuesto una reforma laboral que precisamente rompe la negociación colectiva pone en manos de la patronal lo que es la negociación colectiva y se hizo expresamente para que se diera esta situación de precariedad y descenso de los salarios hombre me parece que es un poco

que es distinta de nuestra estructura productiva de nuestro modelo productivo de las necesidades de nuestro tejido productivo y también en función de la voluntad democrática no solo de los trabajadores y trabajadoras

de esta cámara para que podamos legislar democráticamente el modelo de relaciones laborales que queremos

y no efectivamente lo digo y lo reitero no el modelo actual que con el respaldo del gobierno vasco está defendiendo los intereses de una elite porque me mencionan una y otra vez el acuerdo a que llegamos a instancias de una propuesta de euskal herria bildu

un acuerdo que pedía la subida generalizada de salarios y pregunto una y otra vez quién

quién los sindicatos o la patronal quién tiene esa responsabilidad a quién hay que presionar

a quién hay que buscar como aliado para que se recuperen derechos y para que se recuperen salarios

la complicidad con confebask que es la responsable de que se esté dando esta situación en el ámbito salarial y en el resto de condiciones laborales o sea que asuma la responsabilidad de sus actos están alineados

no en beneficio de aquello que pueda ser legítimo como crear empleo o impulsar la eficiencia de las empresas sino en no repartir la riqueza creada y en aprovecharse de la normativa vigente

para actuar en detrimento de los intereses de la mayoría de los trabajadores eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea en nuestra primera intervención ya ha quedado claro

fruto de las elecciones sindicales legítimas y democráticas

que rechazarlo e invitar al gobierno a repensar su elaboración haciendo caso y escuchando a las numerosas protestas de las organizaciones sindicales la institucionalización del diálogo social es pero no de esta manera estamos de acuerdo con garantizar y dar seguridad al diálogo social pero hay que hacerlo bien el documento

apoyadas por la patronal gobierno y un solo sindicato sea el que sea nosotras no podemos estar de acuerdo con esto independientemente de cual sea el sindicato porque eso permite tomar decisiones

más cuando ningún sindicato vasco tiene la mayoría absoluta ninguno

de la representación sindical y señora castelo no es cierto que el decreto diga que el acuerdo es con tres partes

eso no es la representación de esa parte cuando una de las partes está compuesta por la representación de las trabajadoras elegidas en elecciones sindicales democráticas tenemos

nos guste más o nos guste menos y con respecto al derecho a veto por nuestra parte ninguno somos conscientes de que los sindicatos tienen sus estrategias pero independientemente que algunas nos gusten más o otras nos gusten menos

negarnos a esa representatividad y además el pnv habla mucho de principio democrático pero es que en esta ocasión no le vale

pero los gobiernos no pueden respaldar fórmulas que se saltan la representación emanada de las selecciones sindicales

otorgada por el parlamento la patronal porque les eligen los empresarios y los sindicatos cada uno representa la confianza

son los deseables pero los acuerdos con la parte sindical mutilada no lo son

y si alguien utiliza su representación a modo de veto que sean las trabajadoras las que decidan quién les representa mejor pero no se salten esa representatividad

compartir con respecto a las enmiendas que han presentado los partidos que apoyan al gobierno es evidente

no hacen más que defender y refutar las propias políticas neoliberales y dejan muy claro el marco de relaciones laborales

defienden un marco que niega la realidad sindical en euskadi y que intenta pasar por encima de la representatividad democrática y en cuanto a la propuesta inicial

la mitad de su propuesta está centrada en la creación de un ámbito vasco de relaciones laborales desde elkarrekin podemos creemos que ya existe un marco de ámbito vasco como tal y aunque por supuesto hay que mejorarlo entendemos que sí existe y que no se puede mezclar muchas veces lo político y que hay que priorizar lo social por encima de lo territorial

mentar de alguna forma a las bases para un nuevo estatus que se sostiene únicamente por dos de los cinco partidos de la cámara no

para nuestro grupo parlamentario se trata de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para todas las trabajadoras en euskadi para ello es necesario el diálogo social respetando los resultados legítimos elegidos democráticamente en las elecciones sindicales

bueno vamos a ver estamos todos de acuerdo en que la mejor manera o el mejor proceso para

hasta ahí no tenemos problema estamos todos de acuerdo o la gran mayoría en que el modelo tripartito es por el que apostaríamos bien

derecho de veto no estamos de acuerdo porque voy a recordarles que el artículo cuatro todas las centrales sindicales más representativas del ámbito vasco lógicamente teniendo en cuenta la actitud de los últimos años de algunas de ellas se expresa de la siguiente manera forman parte de la composición de la mesa las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco que acepten integrarse y participar de forma activa en ella

dónde está aquí ninguna exclusión si alguien se quiere excluir se llama autoexclusión por tanto cuál es la forma de

punto uno que suele ser el primero el que marca el parámetro general con carácter general los acuerdos de la mesa se adoptarán por unanimidad

pero lógicamente también para establecer la posibilidad de llegar a acuerdos

cuando una propuesta de acuerdo cuente con la conformidad de los representantes del gobierno de la organización empresarial integrante de la mesa o de las integrantes porque también se abre la posibilidad a que se de representación a nuevas patronales y eso se les ha olvidado a todos ustedes decirlo y de alguna o algunas

de la mesa no como acuerdo como decisión de la mesa a efectos de que se desarrollen políticas o actuaciones posteriores relacionadas con la materia que se trate de manera a concertar

el peligro lo ven otros otros que llevan a mi modo de ver

la defensa de los derechos de las y los trabajadores para la consecución de esa mejora de la calidad del empleo

de esa mejora en la situación de la brecha salarial por cierto todos con grupos de trabajo en los que tampoco quieren participar

tripartita no vivan ustedes del acuerdo que se firmó de forma bilateral ese acuerdo se reconoció su error en la tramitación

para que pueda realizarse se lo dijimos alguien no nos creyó nos dijo que estaba perdiendo la confianza y la creencia y yo pensando que hoy intervenía decía le voy a hablar de santo tomás no me ha salido a la tribuna no puedo utilizarlo pero sabe perfectamente por qué se lo decía

apostamos por la concertación tripartita pero de una forma equilibrada y democrática no creemos que la única forma de adoptar acuerdos sea la unanimidad no estamos pensando en eso respeta usted su autonomía a quienes ya están en la mesa pero niega a quien no quiere

yo no le he oído decir eso y yo cuando le digo que usted trabaja al dictado de algunos y me cuestiona a mí mi autonomía

cuando hacemos acuerdos pero a mí no me canean después desde ningún sitio y usted lo que ha hecho hoy aquí lo que nos ha traído es una proposición no de ley

sigue exactamente lo que dice el punto seis de la alegación presentada por una de las centrales sindicales y usted lo sabe perfectamente como lo sé yo porque los dos

y se lo digo ahora es que las centrales sindicales nacionalistas que

vengan a la mesa de diálogo social y desde allí hagan defensa también de las posiciones de defensa de los trabajadores a los que representan

con su convenio decaído y sin protección alguna que algunos están viéndose beneficiados de la negociación a nivel estatal por carencia de negociación en el país vasco y aquí las centrales que tienen mayor responsabilidad en la falta de llegar acuerdos sabe usted perfectamente como yo y lo dice el informe del consejo de relaciones laborales no son precisamente

en la mesa de diálogo social por tanto concertación sí tripartita también entre todos también pero con voluntad de todos de aportar y participar en los órganos que se crean para ello

efectivamente señor casanova para mí la insistencia es un valor es un valor usted es muy insistente y para mí es un valor estaré encantado de seguir debatiendo sobre esta cuestión

cuatro pues más o menos los resultados no han sido malos

también es algo que valoro mucho el rigor y usted es insistente pero más bien poco riguroso y no me refiero en este sentido a ese final que siempre hace en

alineado con no sé quién dependiente de no sé cuántos condescendiente con no sé qué otro realmente me quiero referir a cuestiones

que esas coletillas finales y serían tres una sería la metodología la participación metodología de participación

que decía que no se ha garantizado la participación en esta concreta cuestión bueno objetivamente objetivamente han presentado alegaciones yo lo que veo es que han presentado alegaciones pero la participación es mucho más que eso y lo decía la señora castelo ahora la participación es mucho más que eso la metodología de participación es más que eso y ahí hay que estar yo

que todos fuesemos tremendamente participativos si hay pero hay algunos de nosotros y no me refiero a esta cámara y todos sabemos a quién que no participamos o que no participan

el objetivo que esto pretende y usted decía algo que me parece grave decía que el objetivo que persigue este gobierno lo ha dicho y pone por escrito también en

justificación el objetivo que persigue este gobierno es entrar en confrontación con los sindicatos usted realmente se cree eso usted cree que este gobierno tiene ese objetivo bueno a ver me enseña

no sé si llamarlo panfleto en el cual me enseña que recoge las alegaciones de un bueno me da igual pero realmente me parece

inadecuado me parece tremendamente inadecuado y pensar de forma diferente porque nosotros pensamos de forma diferente y presentar unas alegaciones

de modificar de enriquecer un texto me parece una cosa pero empezar diciendo lo que se dice

de esa publicación voy a llamarle me parece tremendamente inadecuado y que no ayuda a nada

no es el objetivo del gobierno no es el objetivo del gobierno con la confrontación con los sindicatos

del gobierno es a través del diálogo social promover el consenso sí ese sí y en esa publicación que usted me enseña aparece ese como un objetivo también

para mí perseguir el consenso es un objetivo es un buen objetivo y en tercer lugar los resultados dice usted

no ha obtenido ningún resultado resultados cero ningún fruto dice bueno eso es objetivamente incierto el hecho como se le decía ahora mismo de que hoy se esté trabajando en grupos de trabajos sectoriales en ámbitos como la situación de las empresas en crisis la siniestralidad la igualdad y la calidad del empleo o la formación y la cualificación para el empleo ya es un fruto

en sí mismo pero es que además por ponerle un ejemplo en la reunión de la mesa el dieciocho de julio del diecisiete se trataron temas con la institucionalización

no es un fruto no no bien tampoco es fruto el acuerdo interprofesional de diecisiete de enero que tiene antecedente pero tiene un antecedente

con el no eso no es no tiene un antecedente ese acuerdo

frutos metodología objetivo y frutos sea riguroso y puede ser insistente también eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor casanova yo confiaba realmente en que retirara su iniciativa

por continuar esa tónica que hemos tenido esta mañana de repartir mantequilla con el gobierno que parece que está engrasando tanto las relaciones

que están en marcha efectivamente es cierto señor casanova

ni pueden votar libremente por las condiciones por la normativa por la ausencia de representantes por trabajar en centros de trabajos muy pequeños por ser escasa la plantilla

votar libremente como no se pudo votar en esas otras elecciones que ustedes ponían en duda a las que yo le hacía referencia en mi primera intervención las de diciembre de mil novecientos setenta y ocho esas

ese espíritu de respuesta democrática ante los acontecimientos adversos y de respeto a los minoritarios como ha tenido hacia ugt y comisiones obreras que también está bien qué caramba

reconocerlas pero lo mismo que le hago halagos le voy a hacer un feo me ha parecido de muy mal gusto señor casanova se lo digo sinceramente que usted ponga encima de la mesa la foto de los acuerdos de diálogo entre gobierno y patronal cuando medio gobierno no está en esa foto no está en los acuerdos

y el gobierno del país vasco y entre el gobierno del país vasco yo no veía ningún consejero socialista y eso que la consejera aquí presente es la que se supone que tiene que recibir las competencias tan cacareadas y tan pedidas las más importantes pero no estaba en esa fotografía

discurso de hoy y no le he querido sacar en mi primera intervención porque no me parecía lo correcto pero lo ha hecho usted y le afeo por ese comportamiento señor casanova exactamente igual que le afeo por decir que no existe confrontación

o uno de los sindicatos mayoritarios nacionalistas o en general todos los sindicatos con la patronal y con el gobierno porque no es verdad claro que existe confrontación

porque no hay diálogo y porque hay algunos que llevan mucho tiempo intentando dinamitar el diálogo porque hay algunos que no intentan buscar acuerdos porque hay algunos

de tener la legitimidad de la representación de los trabajadores y lo que hacen es defender sus intereses de grupo los suyos propios su ideología política

sus intereses como grupo como sindicato no de los trabajadores y eso nos lleva a ese

yo desde que puse el pie en esta casa me he encontrado con las tortas que hay entre el gobierno y los sindicatos entre la patronal y los sindicatos y antes de entrar en esta casa en otras casas que estuve y antes simplemente con los periódicos y ver los telediarios yo creo que las mesas de diálogo social son muy importantes pero el problema no es un proyecto o un anteproyecto o un borrador de decreto de institucionalización de ese diálogo social el problema es la voluntad de ausencia de diálogo y de búsqueda de confrontación y no desde luego la de defender los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos en general muchas gracias

esaten du el informe base para la elaboración de la nueva ley de aportaciones preceptivos según la ley municipal reprocha que el fomento del euskera y la financiación

porque se aborda desde todos los niveles institucionales

sakon egiteko baina ez bakarrik ala para pasarlo para que vaya allí para no hacer nada

de la violencia contra las mujeres la previsión de la remisión de este proyecto de ley está contemplada en el calendario legislativo sí que es cierto que

remitir este proyecto de ley a la cámara antes de finalizar este año urte hau baino lehenago bidaltzea lege proiektu hau legebiltzarrera baina gero egia da

lege proiektu hau berriro bidaltzea por otra parte otro de los puntos

es el análisis de las medidas del pacto de estado contra la violencia de género

fuesen de aplicación en euskadi este tema fue también tratado lo abordamos en otro debate específico sobre esta cuestión y también había un mandato específico al gobierno para que remitiera

susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma a nadie se le escapa que fue desde luego un hito la aprobación de la ley integral

en este pacto contra la violencia de género aprobado prácticamente por la totalidad de los grupos con la abstención

las medidas contempladas en esta ley y por otra parte consideramos importante reforzar todos los programas que tienen que ver con la prevención sensibilización protección y atención a las víctimas de violencia de género así como

decía hemos llegado a un acuerdo con los grupos que apoyan al gobierno en relación a que efectivamente se remita dicho proyecto de ley que está pendiente que ya estaba contemplado en el calendario legislativo que también acuerdos concretos en esta cámara acordamos o dijimos al gobierno que tenía que enviarlo antes de finalizar el periodo de sesiones de dos mil dieciocho y esos acuerdos no se han cumplido hasta la fecha

relación al plan de las medidas del estado contra la violencia de género el pacto

y por otra parte también otra de las peticiones del partido popular en relación a reforzar los programas y revisar y mejorar los protocolos sí que es cierto bueno me hubiera gustado que hubiera habido un acuerdo por unanimidad no ha sido posible

parece ser que se van a abstener explicarán sus razones eh bildu no tenía ninguna enmienda

y por otra parte también hemos incorporado y hago referencia en un punto a que se diera cumplimiento a los acuerdos aprobados

el pasado pleno también debatimos una iniciativa del grupo elkarrekin podemos en esta cámara y en ese sentido también hemos

párrafo específico para que se cumplan los acuerdos aprobados en relación a la vigente

debatidos y aprobados en la presente legislatura que es lo que planteaba elkarrekin podemos en su enmienda

cuando hemos contemplado la petición de su enmienda y no suscribe el acuerdo pero bueno

otra vez instemos por una parte es positivo el volver a recordar al gobierno vasco que el proyecto de ley de violencia contra las mujeres

vuelto a incorporar en esta iniciativa y esperemos en ese sentido

pues se cumpla ese mandato y llegue

lo antes posible para su tramitación puesto que estamos en la mitad de la legislatura en mitad de la legislatura y estamos hablando de un proyecto de ley con todos los informes que acompañan a un proyecto de ley que son preceptivos y por lo tanto si se alarga mucho este tema

al final una ley aprobada por esta cámara en relación

la ciudadanía vasca y por eso creo que es conveniente volver a espolear al gobierno y volver a recordar al gobierno que este tema es un tema prioritario y además así lo dijo el propio lehendakari en su

por lo tanto esperemos que esta vez ya sea la definitiva y no tengamos que volver a traer una iniciativa a esta cámara

carece de medidas concretas que faciliten modifiquen o cambien las actuales políticas públicas para acabar con la desigualdad y en consecuencia directa con las violencias machistas en la iniciativa del grupo parlamentario del pp se insta al gobierno a remitir a la cámara la propuesta normativa para erradicación de las violencias machistas

sinceramente no aporta nada nuevo también insta a presentar un plan implementando

las medidas del pacto de estado contra la violencia de genero a iniciativa de nuestro grupo parlamentario se alcanzó un acuerdo por unanimidad en esta cámara

en euskadi mucho más completo que el punto que se propone hoy así que tampoco aporta usted nada nuevo

le recuerdo que tenemos al menos una decena de acuerdos con medidas concretas para revisar y mejorar los programas de apoyo a las víctimas así que el tercer punto pues tampoco propone nada y han añadido un cuarto en el que solicitan que se cumplan los diversos acuerdos aprobados en relación a las violencias machistas en la presente legislatura no está mal insistir como le decía antes pero tampoco aporta

entonces nosotras nos preguntamos cuál es el objetivo de esta iniciativa que no aporta nada nuevo no proponen nada que no se haya debatido

o que no se haya acordado ya en este parlamento así que a la vista de la iniciativa parece más una propuesta que ustedes han hecho

acostumbradas desde el gobierno que a una iniciativa de la oposición de hecho la enmienda

un calco de su iniciativa original parece que se han sentido

iniciativa entendemos que la situación de las mujeres y las violencias machistas exigen responsabilidad e iniciativas que intenten señora garrido ir al fondo de la cuestión no generalidades de cara a la galería que no suman bajo nuestro punto de vista en un tema tan serio como el que nos ocupa tenemos la impresión de que ustedes necesitan blanquear su imagen de cara a las mujeres porque han sido y continúan siendo

por todo ello nuestro grupo parlamentario se va a abstener desde elkarrekin podemos hemos presentado cuarenta y cinco iniciativas específicas de violencias machistas a las que tenemos que sumar todas las iniciativas específicas para la igualdad y también todos aquellos procesos parlamentarios en los que hemos incorporado a través de propuestas concretas

sea intrínseca a cualquier política pública en nuestra enmienda hemos considerado oportuno recoger los acuerdos alcanzados por unanimidad a través de iniciativas de elkarrekin podemos así que vamos a recordar los múltiples compromisos que el gobierno tiene pendientes a instancia de este parlamento

para mejorar la atención a mujeres en situación de violencias machistas todos los acuerdos que mencionaré están incluidos en la enmienda que presentamos

en mayo de dos mil diecisiete se acordó una iniciativa relativa a la modificación de prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia debido a que esta prestación no está llegando a todas las mujeres entre otras cosas porque la burocracia y los requisitos que tienen que cumplir son una autentica carrera de obstáculos también en mayo de dos mil diecisiete hace más de un año a iniciativa de mi grupo parlamentario se llegó a un acuerdo relativo a eventos deportivos libres de violencias simbólicas de las mujeres

implementación en octubre de dos mil diecisiete se alcanzó un acuerdo por unanimidad en esta cámara a partir de una moción

un plan de mejoras para asegurar el acceso a la justicia de las mujeres niños niñas y adolescentes en este parlamento no se ha presentado

este año en el informe de impacto de género que acompaña al proyecto de presupuestos dos mil diecinueve no hemos encontrado una sola partida para políticas específicas de igualdad de la viceconsejería de justicia

un acuerdo relativo a violencias machistas y departamento de seguridad y ahí se instaba a revisar los sistemas de información del departamento

lo que significa que el número de denuncias que publican anualmente son menos de las que realmente se presentan por violencias machistas en mayo de este mismo año en dos mil dieciocho este parlamento ya llegó a un acuerdo sobre una implementación del pacto de estado contra la violencia de género como ya le he comentado antes señora garrido

a realizar un plan de implementación en el marco de las competencias autonómicas forales y municipales así como que se garantice la participación de organizaciones de mujeres y feministas

del proyecto de ley sobre violencias machistas desde mayo está pendiente que tengamos novedades del gobierno sobre los avances del cumplimiento de este acuerdo también en mayo de dos mil dieciocho se alcanzó un acuerdo relativo a crear

en situaciones de urgencia entendemos que estarán todas de acuerdo con que se lleven adelante los acuerdos alcanzados por unanimidad en el parlamento vasco así que entendemos que todas ustedes votarán a favor de nuestra enmienda

garrido comprenderá que su iniciativa nos parezca absolutamente insuficiente más bien un brindis al sol en definitiva nuestro grupo no votará en contra pero no vamos a votar a un acuerdo

erradicación de las violencias machistas besterik ez eskerrik asko

bueno efectivamente volvemos a otro pleno para hablar del tema de la violencia de género efectivamente

elkarrekin podemos ha presentado cuarenta y cinco iniciativas en torno a este tema y yo creo que tan importante son las iniciativas que presenta elkarrekin podemos como

en estos temas al partido popular pero creo que no debiéramos de menospreciar ninguna en muchas ocasiones presentamos iniciativas parlamentarias los partidos en este caso de la oposición y muchas veces los acuerdos que se firman a unos u a otros nos parecen insuficientes pero creo que muchas veces debiéramos de poner

de la igualdad y el tema de la violencia machista no debiéramos de plantearlo como una cuestión de mayorías sino como una cuestión

todos llegar a acuerdos como en algunas ocasiones hemos logrado que fueran por unanimidad es verdad que se han presentado muchas iniciativas es verdad que el grupo elkarrekin podemos planteaba en su enmienda transaccional la necesidad de volver a repetir o a manifestar el acuerdo

una vez debatidas tantas veces las iniciativas creo que

y yo creo que ya lo que debemos de esperar es la ley la ley

este asunto creo que hay un compromiso por parte del gobierno vasco en traerla formaba parte del calendario legislativo

en todas las iniciativas se ha planteado el compromiso por parte del gobierno de traerla y yo creo que es ahora

todos en trabajar y en ser capaces de lograr la mejor ley posible intentar que sea lograda por unanimidad y como digo alejarnos de esos juegos de mayorías porque creo que

sea acordado por unanimidad y por tanto creo que debiéramos de huir de repetirnos en que estamos en contra y poner en valor lo que nos une más allá de lo que nos separa porque como digo

pero como digo para el grupo socialista la enmienda transaccional acodada recoge un poco lo que planteaban todos los portavoces

el pacto de estado que ya se debatió en su momento también es recogido dar cumplimiento a los diversos acuerdos

la enmienda lo planteamos de otra y reforzar los programas creo que también no hay ningún grupo parlamentario que pueda plantear su posición contraria a lo mismo

por quién presenta una iniciativa o quién no la presenta pero como digo creo que a partir de ahora la ley debe ser el objetivo y espero que seamos capaces de traerla

bueno voy a ver si con esta segunda intervención puedo convencer a la señora

que si me empeño yo creo que sí lo voy a conseguir bueno en cualquier caso

la disposición a acordar y sobre todo también la especial referencia de la señora rojo a la importancia de que el gobierno remita un proyecto de ley en relación a la lucha de la violencia contra las mujeres en cuanto a la señora

es que en este caso usted no ha sido la proponente se lo digo con todo el cariño y con todo respeto pero también tengo que decirle que usted desde luego no tiene el monopolio de las iniciativas en esta cámara claro me dice que no se contemplan medidas concretas en la remisión del proyecto de ley

con las medidas que se pueden implantar en euskadi del pacto contra la violencia de género que se remitan a la cámara todos los acuerdos alcanzados en esta cámara en relación

no se contemplan medidas concretas porque y solo proponen algo las iniciativas cuando ustedes las proponen y aportan algo también las iniciativas cuando ustedes las presentan

y los grupos que estamos en la oposición pues tenemos que

para que remita los compromisos y que cumpla mejor dicho los compromisos adquiridos con esta cámara por una parte está el compromiso adquirido en el calendario legislativo que

este cuatrimestre y por otra parte los acuerdos alcanzados en esta cámara que acortaban dicho plazo al primer periodo de sesiones

insta al gobierno vasco a cumplir cada uno de los acuerdos que se han alcanzado en esta cámara en relación en este tema y cuando lo pedimos en la enmienda transaccional nos dice que no le parece suficiente es que

o me lo explica mejor pero estoy un poco espesa ya hoy a estas horas de la tarde con un día un poco

y mire voy a acabar porque sus señorías están cansados ha sido un día largo pero sí que le tengo que recordar que precisamente la responsabilidad

cuando los ciudadanos le ponen en el lugar para actuar y para

se han reforzado todos los instrumentos administrativos y jurisdiccionales se han tipificado nuevos delitos en el código penal se ha aprobado el estatuto de víctima del delito

se han ampliado las competencias de los juzgados de violencia contra la mujer se han arbitrado nuevos mecanismos de coordinación se ha establecido una convocatoria

le preocupa mucho se ha incrementado el complemento de las pensiones por maternidad

se ha aprobado un plan de igualdad de oportunidades con la mayor consignación presupuestaria de toda la historia con ciento veintisiete millónes de euros con ciento veinticuatro medidas la estrategia nacional para la erradicación de la violencia esto es ejercer la responsabilidad

pues les digo que también miren con el cariño con cariño y con la atención por lo menos que se merece la iniciativa presentada por el grupo popular en el congreso de los diputados para modificar

de la violencia de género para incluir medidas concretas del pacto de estado es en el que ustedes se abstuvieron

ley que es del dos mil cuatro se ha quedado un tanto obsoleta en relación a algunas cuestiones

que extiende la violencia machista a otro tipo de violencias que están fuera de la pareja como la sexual o la inclusión también en esta iniciativa que pedimos como víctimas de la violencia machista

a las madres creo que este es un tema importante o que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de interponer la correspondiente denuncia que sirva el reconocimiento

de que haya una sentencia condenatoria por este delito una orden de protección una resolución judicial que contemple alguna medida cautelar para la víctima un informe de la fiscalía que apunte a la existencia de indicios relacionados con la violencia

que se ejerce la responsabilidad cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición como es el caso que está haciendo el partido popular y eso es lo que ahora nosotros también hacemos desde la oposición

escrupulosamente los acuerdos alcanzados en esta cámara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

señora rojo no la ley efectivamente puede ser un principio pero desde luego una ley sin recursos

entonces es bueno que tengamos una nueva ley es bueno que venga

pero también es bueno que esa ley la respalde unos buenos presupuestos para que se cumpla íntegramente esa ley señora garrido

no nos abstenemos o no nos parece bien su iniciativa porque la presente el pp simplemente

que en cierto modo es una especie de lavado de cara por parte de su partido porque además me habla de responsabilidad mire señora garrido ustedes presentaron un recurso de

inconstitucionalidad a la ley orgánica tres barra dos mil siete de veintidós de marzo para la igualdad efectiva

ustedes votaron en contra de la ley de igualdad de euskadi ustedes se opusieron a la creación de juzgados especializados en violencia de género y votaron a regañadientes a favor

ha declarado que si gobierna quiere volver a la ley del aborto del ochenta y cinco

porque desde luego a nosotras no nos lo parece porque el aborto es un derecho conclusión

señora garrido hablar del tema que parezca que se ocupan que toman iniciativa pero sin mover nada sin proponer cambios ni mejoras reales y todo esto porque

y ustedes no saben ni dónde meterse eskerrik asko arana

zurea da hitza bertatik sí gracias presidenta desde el escaño si me lo permite

primero un proyecto de ley no es únicamente un papel creo que es mucho más porque de momento marca la voluntad política de un gobierno si no hay proyecto de ley que trae un gobierno ni siquiera hay voluntad por lo tanto creo que este gobierno queda clara la voluntad de traer el proyecto

económicos eso se ve en las negociaciones presupuestarias está muy bien hacer discursos políticos que si no dotamos de financiación no sirven para nada

de acuerdo con usted por eso cuando el partido popular llevó al congreso de los diputados el pacto de estado unos lo dejaron vacío de contenido político y llegamos los socialistas para poner el dinero que hacía falta para hacer esas políticas efectivas

de eso no hace falta que nos explique nada eskerrik asko rojo

se comprometió a aportar garantías y derechos de carácter universal contra la discriminación no obstante las políticas y las leyes discriminatorias israelís dirigidas expresamente contra la población

palestina de jerusalén tienen como objetico el traslado forzoso de población palestina de jerusalén

por parte de la administración trump ha alentado al gobierno israelí a intensificar aún más la vulneración de los derechos del pueblo palestino